gracias señora presidenta la moción que presentamos desde el grupo popular es consecuencia de la interpelación que hacíamos al señor consejero

preguntábamos al señor consejero por qué osatek

que tiene encomendada la gestión del servicio de teleasistencia dice

atesora un desarrollo potencial casi ilimitado cuando este servicio está específicamente definido de manera clara y concreta en la ley de servicios sociales en esta ley se especifica los instrumentos para promover y garantizar el derecho a los servicios sociales

prestar uno de ellos es la teleasistencia y es en ese decreto de teleasistencia donde se define como un servicio técnico de apoyo

de una línea telefónica y con un equipo de comunicación disponer de un servicio de atención permanente las veinticuatro horas del día trescientos sesenta y cinco días del año atendido por personas específicamente preparadas que puedan dar respuesta en determinados momentos de emergencia

recoge también en el documento del decreto de la carta de servicios donde se especifica que para cumplir el servicio debe contar con un servicio de contacto los dispositivos y los terminales un registro de datos una atención

para garantizar en caso de necesidad la presencia en el lugar o en domicilio del usuario y cuáles son los objetivos

e integración en el entorno familiar y social de las personas con falta de autonomía y que pueden necesitar supervisión ofrecer

que mejore su calidad de vida y las aporte seguridad ofrecer

asistenciales y ofrecer un soporte a la red socio familiar de apoyo que asume el cuidado familiar de las personas usuarias

el servicio de teleasistencia en la cartera de servicios aquí no se dice que sea la administración quien deba asumir los cuidados del usuario no dice que sea la administración la proveedora

si tenemos definido de manera clara y concreta por ley por decreto que el servicio de teleasistencia es un servicio a través de una línea telefónica mediante un equipo de comunicación cómo es posible que el directo de osatek

lo dijo en cámara parlamentaria y también el señor consejero el otro día

dicen que es un servicio a domicilio no

en la cartera de servicios está definido el servicio de teleasistencia

no podemos confundir esos términos porque eso nos lleva a hacer lo que no corresponde y si está definido nos tendremos que atener

y en el decreto decía el señor consejero en la respuesta a la interpelación proveedores únicos de servicios socio sanitarios es que la administración no debe ser proveedora no debe ser proveedora creo que hay términos que merecen la pena ajustarlos

han puesto detectores de gas todo ello de manera opaca sin ninguna concurrencia pública todo ello de manera

señor consejero en la respuesta nos llamaba teleasistencia avanzada mire yo perdone que le diga pero creo que es una intromisión es más bien un negocio opaco lo que usted llama teleasistencia avanzada

y es una competencia desleal hacia sectores

de esos elementos por lo tanto creo que eso no es lo que corresponde potenciar a la administración no creo que eso lo que dice la ley

ni lo dice la cartera de servicios creemos que es una intromisión en otras actividades que son proveedores efectivamente pero la administración no lo puede hacer y menos de manera opaca como se está haciendo en la cartera de servicios se dice expresamente que el servicio de teleasistencia debe ofrecer

eso sí pero no ser proveedora no hay que mejorar la calidad

y pueden ser intermediarios pero no proveedores esto no es un mercado esto no es un negocio creo que se me entiende bien

que aporte seguridad y calidad de vida al usuario esto es lo que dice la ley de servicios sociales

documentos que son frutos de un acuerdo importante primero de esta cámara de la ley de servicios donde hay aportaciones enmiendas

no era voluntad voluntad de quien aprobó esa ley que fue esta cámara de que se hiciera una teleasistencia avanzada como ustedes interpretan no porque sino estaría reflejado tampoco de quien hizo el decreto porque sino estaría reflejado y tampoco quien acordó la cartera de servicios que fue el gobierno y las diputaciones y ustedes deben saber que eso fue un trámite una negociación

y que cada palabra tiene un por qué y cada coma también y cada punto también y eso

por lo tanto creo que no corresponde a la administración potenciar eso por eso nosotros

de manera ajustada a la ley me decía el señor consejero el otro día que claro a veces criticamos que no cumplimos la que el gobierno no cumple la ley que se denuncia que no llegan a ser el cien por ciento de lo que dice la ley

la ley dice lo que dice y hay que ajustarse a lo que la ley ha querido decir y quien ha aprobado esa ley el regulador es lo que ha querido

cuando nos extralimitamos primero habrá que saber y dar una explicación del porqué mirar a quien estoy perjudicando que también habrá que mirarlo y luego primero modificamos la ley y luego lo que hagamos será ajustada a derecho

la obligación que corresponde a la administración nosotros presentamos una moción los grupos han presentado enmiendas hemos llegado a un acuerdo entre grupo socialista grupo nacionalistas vascos y grupo popular la enmienda

vamos a recalcar instamos al gobierno vasco

que regula el servicio público de teleasistencia así como el artículo setenta y dos

especialmente en lo referente a definición objetivos y medios con los que debe contar el servicio

también le pedimos al gobierno y al departamento de empleo y políticas sociales asuma todas sus competencias en relación con el servicio

en el marco de la cartera de servicios el departamento de empleo

la contratación de los servicios necesarios y el control del cumplimiento estricto de los criterios de calidad establecidos en la contratación para la correcta prestación del servicio garantice pero que no los preste creo que es por lo menos interpretamos desde el grupo popular que hay que diferenciar garantizar a prestar el departamento de empleo y políticas sociales extienda la implantación del servicio de teleasistencia en las zonas rurales sin cobertura

en la respuesta a la interpelación que estaba ampliando

a estas zonas que tienen más dificultad y a otro grupo de personas usuarias potencialmente usuarias pero bueno algún grupo ha considerado oportuno que se recoja también está moción y a nosotros nos ha parecido bien

que cuando hablamos de temas

los usuarios los dependientes los que necesitan el apoyo el apoyo

seamos sensibles sensibles a la hora de atender sus necesidades y de no

tampoco primero algo que usted

valorar la calidad del servicio por la respuesta que da el usuario creo que ese es un parámetro que representa muy poco en este caso muy poco la calidad del servicio

que estas personas dependientes solo el hecho de hacer una llamada y que alguien les responda les parece fantástico

por lo tanto y podemos poner muchísimos ejemplos por lo tanto creo que debe

pero no en concreto la satisfacción del usuario porque el usuario una caricia

satisfactorio y no creo que sea eso el objetivo del servicio creo que bien pero es algo más

del servicio habrá que establecer otros parámetros de calidad porque

con personas mayores y este no debe ser el parámetro que basemos en el que basemos la calidad del servicio

eskerrik asko presidente andrea arratsaldeon denoi de manera muy breve

en manos entonces del partido socialista asume definitivamente la gestión del servicio de teleasistencia contaba entonces con un censo de veintitrés mil setecientos treinta y ocho personas usuarias según las bases de datos facilitadas por las diputaciones forales y el ayuntamiento de vitoria

además se convertía en socio sanitaria permitiendo a las personas usuarias cuando son crónicos y además dependientes tener un único sistema de comunicación con la administración a través de una plataforma tecnológica que preste este servicio de teleasistencia el departamento de empleo y políticas sociales presta los servicios a través de la sociedad pública osatek que tiene la condición

autónoma de euskadi el decreto ciento cuarenta y cuatro barra dos mil once regula todo el sistema de la teleasistencia que define cuales son los perfiles de atención al servicio

personas menores en situación de dependencia reconocida y personas con discapacidad intelectual y grado

y personas con enfermedad mental incluso personas que están en riesgo de exclusión es decir riesgo de aislamiento y soledad en dos mil once el departamento de empleo y asunto sociales dirigido

elaboró un documento de previsiones del servicio a cuatro años

y un siete coma ochenta y tres por ciento de cobertura y para el dos mil quince

según los últimos datos facilitados por osatek a marzo del dos mil quince

con un nivel de cobertura para las personas mayores de sesenta y cinco años del siete coma sesenta y ocho por ciento desde que fue asumida la competencia por el gobierno vasco en dos mil once hasta la fecha el servicio ha crecido de manera importante

se ha ofrecido a todas las personas que así lo han requerido que cumplen con las condiciones exigidas en el decreto regulador y las partidas presupuestarias destinadas al servicio

los y las socialistas valoramos el servicio público de teleasistencia y entendemos que lo importante es que el departamento de empleo y políticas sociales vele

que asuma sus competencias en relación con este servicio que garantice la contratación de los servicios necesarios para la correcta prestación del servicio

de calidad establecidos en la contratación evaluando de manera continua tanto la satisfacción del personal contratado como de las personas usuarias

no cubiertas así como a las personas con discapacidad y a las personas con enfermedad mental en este sentido elaboramos

y bueno ha sido fácil llegar a un entendimiento con el resto de los grupos que habían presentado un texto en base

esa enmienda transada la ha leído la portavoz del partido popular y por mi parte pues nada más darles las gracias a todos y esperemos que el servicio de teleasistencia siga progresando correctamente

la implantación de la teleasistencia en las zonas rurales sin cobertura alcanzar colectivos de discapacidad y salud mental que necesitan atención sanitaria seguridad en el hogar

partiendo de una visión integral de la persona en su entorno y buscando la continuidad en la atención en este contexto se contempla la teleasistencia como un servicio básico y en continua evolución ese es el objeto del decreto de la teleasistencia sobre el que hoy tratamos

independiente fomentando los aspectos relacionados con el cuidado y la autonomía personal y hoy nos encontramos tratando esta moción como ya se ha hablado

formuló al sailburu toña después de estudiar detenidamente el texto de la moción debemos decir que no nos encontrábamos lejos

y para subrayar un efecto de continuidad al entender que hasta ahora desde el gobierno vasco se ha estado realizando efectivamente

las aportaciones al mismo desde el partido socialista a través de la enmienda de la señora sarasua

va en la línea de los retos que el consejero ya nos desarrolló

nos parece además estas aportaciones muy acertadas y creo que la aportación desde nuestra bancada enmarcando el texto en los principios inspiradores de nuestra ley de servicios sociales

en este sentido la referencia o haciendo una referencia a la moción al texto presentado por eh bildu desde nuestro punto de vista desenfoca el debate

cierta cuestión que puede ser interesante lo referido a la calidad que realmente también se recogió en la respuesta de la interpelación por parte del consejero

y creemos que es un texto que no encaja con el discurso que nos hace la señora lópez de ocariz como digo lo que realmente nos produce sorpresa y cierta preocupación es el sentido del discurso que la señora lópez de ocariz realizó el pasado veintiséis de julio y que hoy

señora lópez de ocariz nos propone un salto de vuelta al pasado

de más de cuarenta años atrás construye su discurso señora lópez de ocariz utilizando solamente tres artículos del decreto de teleasistencia tres el dos el cinco y el ocho

y en base a ellos llega a la conclusión de que el gobierno actúa y le cito saltándose la ley saltándose el decreto saltándose la cartera de servicios

no señora lópez de ocariz está muy equivocada el gobierno en todo momento ha cumplido la ley en primer lugar lo que a usted le ha pasado es que ha encuadrado muy mal este asunto en primer lugar ha olvidado todo el cuerpo de la norma ha olvidado

ha olvidado leer el previo a la parte dispositiva el equivalente en los decretos a la exposición de motivos de las leyes donde se recoge el esencial encaje de este decreto con nuestra ley de servicios sociales de dos mil ocho ha olvidado el objeto de la ley ha olvidado el artículo uno ha olvidado el ámbito del artículo tres ha olvidado la modalidad el modelo de financiación y el contenido del servicio los artículos cuatro seis y siete ha olvidado a las personas sí ha olvidado a las personas

con sus derechos y deberes recogidos en los artículos nueve al doce lo ha olvidado prácticamente todo hasta las disposiciones transitorias adicionales y finales todo por eso cuando usted le interpela al consejero y le pregunta y le cito

para continuar diciéndole le pregunto señor consejero porque no lo hemos visto

hoy en la interpelación normal que no lo haya visto normal que no lo haya visto si se hubiese leído los artículos otros artículos más allá de los artículos dos cinco y ocho

en la interpelación ni este discurso hoy aquí léase por favor el artículo numero siete aun así en sus tres artículos favoritos también lo podemos encontrar

leyendo con un poco de atención si vamos a la definición a la que hoy ha vuelto a hacer referencia

no habla de situaciones de necesidad y emergencia social ni de situaciones de necesidad social o emergencia social situaciones de necesidad

ya tenemos una entrada al ámbito sanitario sin ninguna duda en los objetivos del decreto de su artículo favorito cinco favorecer la permanencia como primer objetivo en el objetivo número dos nos habla de ofrecer atención integral

incluso el último de los objetivos el cuatro de este artículo cinco nos habla de ofrecer apoyo al entorno es decir más allá todavía de la atención integral ir a los familiares ir incluso a su entorno dónde está decía usted que no lo hemos visto ahí está en toda la norma en todo el decreto

una cuestión esencial en torno a la aplicación de las normas es la interpretación es un proceso por el que se establece el sentido de una norma

de solo tres artículos que es totalmente insuficiente

y vinculamos esta con sus leyes de referencia fundamentalmente la ley de servicios sociales y en este sentido lo que nosotros hemos aportado al texto transado no tenemos ningún problema para entender que este decreto ayuda a consolidar

cuya prioridad radica en el mantenimiento de las personas en su entorno de vida habitual este enfoque comunitario totalmente aceptado por todos los grupos de este parlamento incluido el suyo supera sistemas anteriores caducos sistemas que establecían compartimientos estancos donde se llevaba a las personas y allí se les prestaban los servicios personas que eran alejadas de su entorno tuvimos un ejemplo una visita usted no pudo estar porque era de la comisión de sanidad y fuimos al hospital y nos enseñaron nos hablaron del caso de una persona de siete años que ingresó allí y salió con setenta y siete hace dos años

usted con la interpretación que hace vuelve a aquellos esquemas da un salto de vuelta al pasado de más setenta años usted reprocha al gobierno

por ir más allá usted confunde saltarse la ley incumplir la ley con desarrollar la ley un ejemplo de saltarse la ley

con nuestro estatuto un ejemplo de desarrollar la ley es lo que el gobierno vasco hace con el servicio de teleasistencia que en sus fases iniciales cumplía lo estrictamente normativo

que se ha realizado ese cumplimiento inicial se interpreta la norma conforme a su dimensión lógica y sistemática la relación que tiene con otras normas de su entorne

usted se ha preguntado que fin último persigue esta norma este decreto

la persona en el centro de la acción acción integral eso persigue acción integral atención integral

sí por supuesto sí y todos los servicios que seamos capaces de dar para potenciar el cuidado y la autonomía de las personas que tienen estas necesidades

que la cumplimos que el gobierno la ha cumplido vamos hacia delante guiándonos por esa brújula el fin de la ley y no hacia atrás como usted propone y vamos hacia delante planteándonos nuevos retos qué servicios les podemos llevar a esas personas sin sacarlas de su entorno

en su comparecencia los retos para el dos mil quince dos mil dieciséis la implantación de la teleasistencia en las zonas rurales sin cobertura esas zonas donde no hay cobertura alcanzar a colectivos de discapacidad lo ha recordado la señora sarasua también vamos hacia ahí alcanzar a colectivos de discapacidad y salud mental que necesitan atención sanitaria

teleasistencia avanzada apoyo a las personas cuidadoras y todo ello manteniendo los valores de calidad constatados y tan bien valorados por nuestra ciudadanía

siguiendo el espíritu de nuestra ley de servicios sociales me gustaría a modo de conclusión citar brevemente al consejero cumplimos la ley decía el consejero

la llenamos la completamos incluso con lo que no está escrito en la ley eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

gracias señora presidenta señor aiartza bueno lo voy a dejar para el final quiero agradecer a la señora sarasua el apoyo a esta iniciativa

que efectivamente algunas de las cosas que ha dicho en cuanto a los trabajadores la calidad del empleo

podríamos hablar en otra iniciativa de verdad porque me ha parecido que algunas cosas sí merece la pena tratarlas y poder acordar

o en fin creo que merece la pena por lo menos debatirlo por lo tanto creo que no era objeto de esta iniciativa y nos ha parecido más oportuno separarlo

nos ha parecido interesante algunas cosas que se recogían en su enmienda señor aiartza yo he retrocedido mucho mire yo le voy a decir

hay que evitar que la teleasistencia se convierta en una oportunidad de negocio en torno al dependiente desde la administración y se lo voy a decir más claramente

le avanzo algo más la ley no permite que sea una oportunidad de negocio pero si hablamos de extralimitarnos la ley puede ser

si vamos a hacer una extralimitación de la ley pues mire la rompemos y hagan lo que quieran me habla de las zonas rurales qué me dice qué necesitan atención sanitaria en las zonas rurales pero cuantas veces

si lo lleva

eskerrik asko señora arrondo dos cuestiones con usted calidad propuestas sobre calidad

parlamentarios la oportunidad de hablar de calidad con el departamento de políticas sociales sobre esta cuestión y nos han traído ratios de calidad y tal yo creo que hay dos sin duda hay dos dimensiones en el ámbito de la calidad la dimensión objetiva o del servicio que se presta que si observamos ese servicio

servicio objetivamente de calidad y luego la percepción la dimensión subjetiva la percepción que tiene la ciudadanía de la calidad

para llevar esa dimensión subjetiva al objetivo se hacen unas proyecciones que se han hecho y los resultados son que la ciudadanía tiene una percepción estupenda del servicio respecto a la otra cuestión que me plantea

siempre hablamos de esa cuestión pero no es la cuestión de valor añadido de esta norma

entonces por eso yo digo que usted desenfoca el debate nada más

cuarenta años setenta años yo creo que señora lópez de ocariz igual me he quedado corto oportunidades de negocio es

no hay ningún problema dígalo usted claro lo que tenga que decir dígalo claro extralimitación de la ley sin embargo esta es una cuestión

no es extralimitarse en la ley es cumplir la ley es seguir cumpliendo la ley es interpretar la ley que es lo que usted no hace para seguirla cumpliendo más allá

eso es interpretar y seguir avanzando en esa ley zonas rurales dice usted dicen ustedes que está super cubierto

decirle al consejero es que hay una buena atención en las zonas rurales

determinan o encuentran en esas valoraciones áreas de mejora es estupendo tener áreas de mejora porque nos permite seguir avanzando

modelo ya superado de atención y el modelo comunitario de atención tanto en el ámbito social y en el ámbito sanitario y lo hemos dicho lo hemos visto

ha hecho multitud de visitas donde básicamente se nos ha explicado lo que es el modelo

es no alejar a las personas de su entorno habitual hay que mantenerlas en el entorno habitual y llevarles ahí los servicios

lo que usted plantea es volver al modelo anterior es decir crear compartimentos estancos tener ahí a las personas y llevarles allí los servicios

con el discurso que usted hace en la interpelación al consejero del pasado veintiséis de junio y con el discurso que ha hecho hoy aquí es lo que usted nos plantea vuelva

con su grupo parlamentario y a ver si en estos entornos socio sanitarios establecen el modelo que quieren yo creo que es

en su grupo parlamentario apostar sin duda alguna como creo que ya llevan apostando muchos años por el modelo comunitario eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

gracias señora presidenta buenas tardes lehendakari consejero

bien voy a ser breve porque hay un acuerdo básico en relación con

fundamento de esta moción está en cuatro cuestiones pues unas declaraciones antes del verano de responsables de

gracias presidenta unas declaraciones de responsables de asociaciones de sangre pues antes del verano en relación con llamar la atención sobre algunas necesidades

salieron informaciones y oímos a esos responsables a hablar que de las reservas se encontraban en ese momento en veinte por ciento por debajo de lo habitual se necesitaban mil trescientos donaciones más de sangre para los meses de verano bueno algunas cuestiones le quedan

eran descripciones de algo que estaba ahí y sobre lo que se podía trabajar también aparte de esas declaraciones de responsables

desde el dos mil diez hablaban del siete por ciento variando de unas comunidades a otras pero bueno que se notaba eso efectivamente

la interpelación al consejero y su respuesta desde luego donde estábamos de acuerdo en el análisis

del doctor vesga del director del centro vasco de transfusiones y tejidos humanos en relación con algunas cuestiones

efectivamente tenemos un buen sistema pero había que

luces de aviso en relación con este tema que es lo que nos ha llevado a presentar una moción es decir

para seguir avanzando algunos datos se ponían sobre la mesa se han puesto sobre la mesa en todos estos fundamentos que yo

ha ido descendiendo el número de donaciones nosotros justificábamos en nuestra moción las épocas la época de navidad

se hacen poco propicias para la donación de sangre también hay otros factores factores laborales de movilidad laboral que también influyen la crisis ha influido la complicada edad de los veinte a los treinta años donde los donantes

retomen esa condición la marcha de jóvenes

cada vez hay gente que vive más desde luego

que tiene que haber más trasfusiones en relación con las necesidades sanitarias y quirúrgicas

hasta ahora en euskadi pero entendemos que se encienden algunas luces de aviso no solo aquí por supuesto pero bueno hay que estar preparados entendemos

es bueno que en relación con estos temas que son básicos esenciales fundamentales en la salud pública en la cirugía y en la salud

en este país pues bueno es bueno que lo hablemos lo hemos abordado muchas veces

también hablábamos hace un momento de visitas parlamentarias pues también lo hemos conocido de primera mano pero bueno yo creo que podemos y debemos

avanzar en la cultura de la donación por eso la moción que presentamos

la moción era presentada por un servidor pero desde luego el grupo nacionalista y el grupo socialista han contribuido esencialmente ha forjar un acuerdo y

seguir pues claro que sí seguir no tenemos ningún problema en reconocer el trabajo que se ha hecho no y además

centro vasco de transfusiones y tejidos humanos

de la sociedad es decir de las hermandades de las asociaciones de donantes de sangre que ha sido trabajo altruista ejemplar en álava bizkaia gipuzkoa no y eso tenemos que reconocerlo

los que somos donantes o los que no lo hemos visto lo hemos vivido siempre sobre todo

superando todos los ranking de donación no solamente en españa sino en europa o en el mundo y bueno debemos decirlo y ponerlo de manifiesto seguir fomentando y apoyando las campañas

de las que ya hemos hablado aquí del centro vasco de transfusiones y tejidos humanos para prestar una atención sanitaria de calidad estén cubiertas en todo momento y no se enciendan esas luces de aviso que se pueden percibir en cualquier momentos también por eso lo fundamental

del año como pueden ser las navidades y las vacaciones de verano hemos visto también se ha reconocido por parte de los responsables de la sanidad que hay

problemáticos de menos donación y creo que es bueno seguir incrementando y seguir apoyando esas campañas y desde luego la moción el segundo punto que

es muy interesante en relación y se complementa al anterior de seguir colaborando con el resto de instituciones son muchas y agentes implicados en el desarrollo de proyectos de investigación

las nuevas tecnologías las nuevas fórmulas medicas o sanitarias a optimizar el uso de componentes sanguíneos y el diseño de elaboración de productos alternativos eficaces y seguros

en el futuro al objeto de seguir mejorando la calidad y seguridad de los tratamientos médicos que precisen los pacientes

desarrolla esta moción una moción que efectivamente lo que quiere es ya lo anunciamos nosotros en la interpelación

en el diálogo que mantuvimos más que en el debate ser proactivos ver que hay algunas luces

en relación en algo tan esencial como es la donación de sangre en euskadi muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

aquí nos ha traído el grupo popular una propuesta en principio razonable pero

totalmente de acuerdo en que se refuercen las campañas de donaciones en determinadas épocas pero hay que ver

pueda haber problemas relativos de falta de sangre en algún momento

porque no creemos que de lo que se esté hablando sea de una falta de solidaridad de la sociedad

lo que ocurre de acuerdo con los datos que tenemos y que nos trasladó tanto el consejero como el director

lo que ocurre sobre todo ha sido la crisis económica la falta de empleo por lo tanto la falta de contacto de las asociaciones

porque han disminuido estos están ahora en su casa es mucho más difícil que tengan la facilidad de donar así como los jóvenes por otro lado

deben de salir fuera y entonces también pierden la facultad la posibilidad de donar

los viajes lo cual también vuelve a dificultar la donación además de que somos una sociedad envejecida que cada vez más

a los sesenta y cinco años y a partir de ese momento por directrices europeas dejan de donar por tanto hay una serie de circunstancias en las que este parlamento ni el gobierno puede actuar porque son circunstancias como décimos o de envejecimiento de la población o de falta de empleo relativo que

facilitar mayor número de donantes por tanto y yo creo que así se ha mencionado que el problema

creemos perdón la cantidad de reservas de sangre hay que garantizar también la calidad y el problema no es en la sociedad de hoy es para el futuro porque recibir un producto biológico procedente de donación humana

no es inocuo puede haber problemas de hecho

de cada utilización de un producto derivada de la solidaridad humana veamos si no

pero una vez conseguida esta hay que seguir dando tratamiento al paciente que ha recibido un trasplante

además de que tenemos ya un paciente crónico al que hay que cuidar toda la vida pero además y vamos a centrarnos solo en la sangre qué ocurre con la sangre pues la sangre es lo mismo es un producto biológico

al cual los servicios de transfusión le han hecho

de elementos conocidos pero no de los desconocidos y de hecho toda la historia de las donaciones de sangre está repleta de consecuencias negativas de problemas y de fallecimientos y sino en el año mil novecientos noventa y dos por ejemplo cuando llego

que contagiamos a un montón de pacientes que recibían transfusiones de sangre para sus problemas de coagulación

una cantidad de muertes y de enfermedades importantes porque cuando llegó el sida no lo olvidemos ni se diagnosticaba

por una transfusión el fallecimiento era la consecuencia más lógica

se está desarrollando o está apareciendo en nuestra sociedad se está desarrollando

porque se desconocía que podía venir una sangre contaminada y eso es lo que ocurre que llega antes la enfermedad que la solución por tanto

es la mejor alternativa de hoy pero no puede ser la del futuro porque no garantiza la seguridad como hemos dicho debido fundamentalmente al cambio de costumbres humanas a la cantidad de movimientos que hay demográficos

los mayores problemas de contaminación de la sangre virus y otras partículas aún menores que los virus como son los priones que son

introducir en el cuerpo de un receptor proveniente de un donante al cual no se le ha estudiado eso porque se desconoce que pueda venir por tanto como décimos

esa es la solución de futuro es para investigar pero también

solidario y sea gratis no es coste cero porque hay que mantener unos servicios hay que hacer unos análisis hay que conservar la sangre hay que cuidarla y hay que distribuirla es decir

por lo tanto no creamos que como es la donación es altruista vaya a ser coste cero la solución como digo de cara al futuro para garantizar

hoy en día está garantizada pero cambian las costumbres y eso se puede volver problemático la solución para garantizar la cantidad de sangre o la cantidad de productos que hay que introducir como tratamiento a pacientes que lo necesitan la cantidad

viene de la sangre artificial de productos que se investiguen de los componentes de la sangre porque a veces no hace falta transfundir la sangre entera basta con transfundir componentes como es por ejemplo el caso de los pacientes que tienen factores de coagulación que precisan

eso es lo que hay que trabajar hoy en día todavía la sangre artificial no existe como tal mejor dicho existe pero no está

pero el camino es ese por eso hemos creído que la oportunidad de hablar de las donaciones de sangre exigía también la mirada un poco más lejos miremos al futuro y hagamos el esfuerzo de los proyectos de investigación en incorporar porque si bien es cara la investigación como digo más cara y más problemático es mantener la situación que
está resuelta y es la mejor alternativa pero no para el futuro nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria orbegozo jauna

gracias presidenta la lucha contra la precariedad laboral

que comprendan políticas sociales políticas económicas políticas fiscales y también un marco laboral que combata la precariedad laboral y que la evite a toda costa

otro instrumento fundamental es reforzar la negociación colectiva pero el papel de los sindicatos y de los interlocutores sociales constitucionalmente atribuido han sufrido un gran deterioro como consecuencia de las políticas de austeridad

de las centrales sindicales y de los interlocutores sociales son algo así como una especie de disfunción en la economía cuando realmente constituyen un poder colectivo

se ha achacado la reforma laboral a la rigidez de las instituciones laborales olvidando que con la misma legislación entre mil novecientos noventa y cinco y dos mil siete

y olvidando también que con la misma legislación se producen tasas de paro muy desiguales en función de los territorios lo cual quiere decir

plantean estos problemas es más bien una cuestión de la organización

por la cual se distingue entre trabajadores productivos y trabajadores no productivos por lo tanto no estamos ante una cuestión estrictamente jurídica

por otra parte pues nos encontramos con que a veces con las estrategias de empleo

parecen querer trasladar a los trabajadores la responsabilidad de crear empleo en última instancia diluyendo la responsabilidad de empresarios y administración

de precariedad laboral un primer grupo lo conforman los contratos de duración determinada a tiempo parcial empleos indirectos como la subcontratación o el trabajo a través de las ett otro grupo serían los contratos temporales que los hay

a tiempo parcial y hasta por llamada telefónica a consecuencia de todo esto hay un incremento del despotismo y de la arbitrariedad en los lugares de trabajo y cada vez se ve como un hecho

por ello es necesario establecer un marco jurídico que desincentive la precariedad

que tienen que ver primeramente con una nueva redacción del estatuto de los trabajadores donde se recojan de verdad derechos fundamentales que luchen contra la precariedad garanticen los salarios alineados con la zona euro

como el derecho a la formación profesional a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo a incorporar la garantía de derechos como la seguridad y salud en el trabajo

acabar con los falsos autónomos esos que trabajan solo para una empresa y considerarlos trabajadores por cuenta ajena

solamente le vincule una actividad formativa y no productiva estas son algunas de las propuestas que recoge el decálogo de los socialistas y en principio pues

ese es el horizonte con el que trabajamos el consejero

a la proponente que efectivamente este es un problema global no es un problema que termina o empieza aquí y

puede hacer algo nosotros si no secundamos la iniciativa de

nos informe ese es el tenor de nuestra enmienda sino que informe a esta cámara de lo que va haciendo

precariedad de manera que el gobierno vasco sí que puede hacer algo en primer lugar puede cumplir acuerdos anteriores de este parlamento y que van en la dirección de un trabajo decente por ejemplo aquel acuerdo del diecisiete de octubre del dos mil trece en el que decíamos que el gobierno desarrollara la ley de contratos del sector público

con especial sujeción a los convenios de aplicación acuerdo que no se ha cumplido aduciendo pues en fin diferentes cuestiones acuerdo del trece de febrero del dos mil catorce en el que le pedíamos que

de base social que quieren transformarse de fundaciones a asociaciones en centros especiales de empleo acuerdo que sigue sin cumplirse

contra la contratación temporal fraudulenta en la que se pedía una campaña en la que se

a la inspección de trabajo en la lucha contra el fraude en la contratación bueno han pasado no más de cuatro o cinco meses pero de esa campaña no sabemos nada entonces creemos que ahí

al gobierno del estado no le planteamos nada al gobierno del estado no le décimos nada porque ya está en funciones y realmente no tiene mucho sentido los socialistas probablemente y casi con toda seguridad estamos llamados a tomar nuevamente responsabilidades de gobierno

nuestro este decálogo que acabamos de exponer el gobierno vasco puede incrementar las medidas en la lucha contra el fraude en la contratación

aplicación por igual a contratistas y subcontratistas evitar el minifundismo empresarial donde predominan las formas de trabajo asalariado no registrado restringir las ayudas públicas coincidimos en eso señora zulaika a las empresas del sector formal que precarizan

bajo las nuevas formas de contratación a no precarizar el empleo público de la administración a fomentar y estimular la negociación colectiva y el diálogo social que son instrumentos esenciales en la consecución de un trabajo decente en definitiva

global como refería el señor consejero hay que actuar localmente y por lo tanto considerando precisamente la dimensión de este problema es por lo que creemos que en la agenda del gobierno debe existir una acción decidida contra esta lacra de la precariedad

lo que tiene que hacer en este tema le pedimos que informe regularmente de su nervio político ante esta problemática que de continuar traerá no solo

no suscribimos como décimos la moción de euskal herria bildu no por que carezca de interés la propuesta tiene y ese es un debate que desde luego que no se ha acaba hoy tiene importancia e identidad suficiente pero que creemos que el gobierno se centre

sean las que sean aquí hemos recordado unas cuantas e incluidos acuerdos parlamentarios que de un modo u otro también son piezas contra la precariedad

a lo que debe ser un empleo digno la enmienda señor maneiro tampoco ha tenido acogida por parte de nuestro grupo porque

que no ha lugar no creemos que el contrato único sea la solución al contrario creemos que parte de premisas falsas como aquella de que

gozan de tantos privilegios y de tantas ventajas que hace falta en origen sí señor maneiro los que plantearon esta cuestión del contrato único era un grupo llamado ciudadanos y el señor garicano que era el que lo defendía con vehemencia

no solo no resuelve nada sino que además jibariza todavía más a los contratos indefinidos y por lo tanto entendemos que la solución no pasa por ahí

mucho de sí pero creemos que no es hoy el día para debatir esa cuestión por eso no le hemos dado

entendido razonable acordar en relación a todo eso nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

evidentemente calificar la situación laboral de la juventud de precaria no es solo justo sino que es también muy necesario es imprescindible

y económica por lo tanto denunciar esta realidad está bien pero es insuficiente criticar la reforma laboral está bien

es insuficiente el plan de empleo del gobierno vasco puede estar bien pero lo cierto es que no se está mostrando eficaz tampoco para acabar con esta lacra las enmiendas de los diferentes grupos e incluso la moción

e incluso la transaccional firmada por los grupos grupo nacionalista vasco y grupo socialista está bien pero

insuficiente y el discurso del señor itxaso también está bien y algunas de las propuestas que ha planteado está bien pero lo cierto es que seguimos en la misma situación en la que estábamos hace algunos meses no parece que sean medidas eficaces para acabar con la precariedad laboral no parece que estén dando los resultados que todos queremos por otro lado en relación a las propuestas

si echamos la vista atrás tampoco podemos decir que en fin la historia socialista cuando ha gobernado el gobierno de españa tampoco haya sido dechado de éxitos en lo que se refiere a la creación de empleo estable digno y de calidad sino más bien

por eso nosotros hemos querido plantear una idea novedosa novedosa hasta cierto punto porque upyd lleva defendiendo esta idea seis años

del contrato único indefinido evidentemente no tenemos ni mucho menos la varita mágica

evidentemente tampoco es la panacea para resolver todos los problemas pero pensamos que es una idea novedosa que no se ha aplicado aún y que podría tener y por eso con ese objetivo hemos planteado esta enmienda de totalidad para decir algo distinto en esta cámara para que no nos quedemos

es instar al gobierno vasco a continuar trabajando o instar al gobierno vasco

creo que es una enmienda de transacción que es muy poco ambiciosa y creo que no plantea ningún tipo de medida concreta para acabar con la precariedad

los resultados de momento no se ven por eso hemos planteado esta enmienda instamos al gobierno de españa a instaurar para todas las nuevas contrataciones y cuando señalo al gobierno de españa me refiero a este o al que venga después

en manos del partido socialista pero en todo caso sea el gobierno de españa que sea lo que nosotros proponemos es instaurar para todas las nuevas contrataciones el contrato único indefinido entre cuyos beneficios cabría citar los siguientes favorecería una relación más estrecha

incentivaría la contratación aumentaría la movilidad y la competitividad mejoraría la formación de los empleados facilitaría la lucha contra el fraude laboral y aportaría claridad y seguridad jurídica y además sería especialmente beneficioso para los jóvenes que buscan y quieren un empleo digno

digno y de calidad estamos viendo que no es la panacea esto que nosotros planteamos por supuesto que noexisten argumentos para defender esta propuesta pensamos que sí merece la pena intentarlo pensamos que sí creo que ha llegado el momento de

resultados mejores que los obtenidos hasta ahora por lo tanto pensamos que se pueden hacer otras cosas es una propuesta solo para euskadi no afectaría a euskadi evidentemente sí beneficiaria a los jóvenes

sin duda existe un fallo endémico de nuestro mercado laboral además de la precariedad y la temporalidad crecientes la dualidad entre trabajadores fijos y temporales este problema se conoce y se arrastra desde hace décadas pero reforma laboral

no se le pone solución por eso pedimos el establecimiento del contrato único indefinido con indemnización creciente por despido ventajas

y empresa incentivaría las inversiones en formación simplificaría la maraña de contratos existentes que es algo que también creo que propone el partido socialista y acabaría con la perniciosa dualidad y la desigualdad que genera entre unos ciudadanos y otros no es una idea original de upyd la medida más reclamada por los economistas de todo el mundo especializados en empleo incluso hubo un tiempo en que era defendida por algún economista español que hoy es

en el gobierno de rajoy el contrato único indefinido que propone upyd contempla una indemnización creciente en dos escalas para despidos procedentes comenzaría en doce días por año trabajado y subiría dos días por año hasta llegar a veinticuatro

a treinta y cuatro días con el mismo incremento anual de dos días además para afrontar una posible indemnización la empresa iría dotando un fondo poco a poco un fondo

cambiar de trabajo más ventajas todos los contratos serían indefinidos desde su firma salvo determinadas excepciones

incentivaría la contratación aumentaría la movilidad y la competitividad mejoraría la formación de los empleados facilitaría la lucha contra el fraude laboral aportaría claridad y seguridad jurídica siendo además como

enmienda un tema especialmente beneficioso para los jóvenes que buscan y quieren

como he señalado el contrato único indefinido favorece una relación más estrecha entre empresa y trabajador a un eventual la empresa no suele ofrecerle formación hoy está pero mañana vendrá otro en cambio cuando el empleado va a estar por tiempo indefinido a ambas partes les interesa aumentar los conocimientos y las habilidades y pensamos también que es la mejor solución para los jóvenes

y moderno que es justo lo que no tenemos su seguridad ira creciendo con el tiempo la empresa estará más incentivada para ofrecerles formación la indemnización portátil facilitará el cambio de trabajo cuando surjan sin temor a perder derechos y desarrollaran sus carreras en una economía más dinámica y competitiva proponemos reservar los contratos temporales

creo sin duda que es una idea que se abrirá camino nosotros llevamos defendiéndola seis años y creemos que es una idea

es una idea de una propuesta perfectamente constitucional

y es una propuesta ampliamente respaldada por distintos economistas de todas las ideologías que creo que comparten algo todos ellos son progresistas

salvo mantenerse de brazos cruzados cualquier cosa salvo insistir en las recetas fracasadas que nos hacen seguir sufriendo la precariedad

el paro y tantos males que acechan no solamente a nuestros jóvenes esta es por lo tanto nuestra propuesta que yo quería explicar en este parlamento ya digo

tendría que ir acompañada de otra serie de medidas de política económica y de cambio de modelo productivo pero creo que es una buena idea

merece la pena al menos estudiarla y tenerla en consideración más que nada por si ustedes llegan al gobierno

ponerla en marcha creo que es una propuesta de verdad

mejorar las cosas gracias eskerrik asko maneiro jauna

cuantitativamente los datos van mejorando y el desafío a futuro irá encaminado a crecer también cualitativamente

empleo de calidad ayer mismo decía el lehendakari que el gobierno vasco debe seguir generando confianza para que el crecimiento sea más sólido y redunde en creación de empleo de calidad este

todas y todos compartimos respecto al empleo juvenil su precaria situación o falta de empleo es una de las prioridades del gobierno vasco

el gobierno ha puesto en marcha varias iniciativas concretas destinadas a mejorar la empleabilidad de este colectivo con indicadores que permiten su posterior valoración iniciativas concretas agrupadas en cuatro ejes apoyo al emprendimiento joven dos formación dual tres primera experiencia laboral cuatro talento joven y en cada uno de dichos ejes con diferentes acciones dentro del de apoyo al emprendimiento joven

cursos de formación y difusión de la economía social para jóvenes júnior cooperativas

y cinco coma cuatro millónes en dos mil quince con una estimación de creación de empleo de setecientos cuarenta directos en el catorce

dentro de este tenemos el programa hezibi y la formación práctica en centros de trabajo

está dotado con cuatro coma nueve millónes de euros en dos mil catorce y uno millón de euros en dos mil quince colaboran el departamento de empleo y el de educación del gobierno vasco mejorando notablemente la empleabilidad de cuarenta mil jóvenes en dos mil catorce

con las siguientes acciones lehen aukera contratación de jóvenes titulados en centros de empresas vascas en el exterior

dotado con cerca de doce millónes de euros en el catorce y diez coma seis millónes este año dos mil quince permitiendo

una primera experiencia laboral directa a cerca de seis mil quinientos jóvenes el año pasado

y cuarto y último eje talento joven becas de internacionalización

movilidad trasnacional para jóvenes apoyo al retorno juvenil

ayudas a personas vascas cooperantes este cuarto eje está dotado con cinco coma siete millónes de euros en el catorce y siete coma dos

duela iragarri du en el pleno de política general el lehendakari anunció que el presupuesto para el año dos mil dieciséis

para impulsar planes de empleo con especial atención al colectivo juvenil además manifestó el compromiso de incrementar en un cincuenta por ciento el presupuesto del programa lehen aukera para favorecer la primera experiencia laboral a través de la incentivación de contratos laborales en prácticas

aquí quiero hacer un inciso en el tema de los contratos laborales en prácticas porque es cierto que a veces

de que la contratación sean prácticas pero a su vez también se quejan porque a veces se exige experiencia laboral que no tienen por lo tanto nosotros entendemos que está bien el impulsar los contratos laborales en prácticas por lo tanto el gobierno está trabajando impulsando medidas concretas para facilitar la empleabilidad de los y las jóvenes hasieran esan dugun bezala oraindik

más allá de la crítica de la reforma laboral del estado y sus consecuencias el gobierno vasco está siendo proactivo programas y medidas concretas que tienen su reflejo en la realidad por medio de acciones y partidas presupuestarias concretas que inciden todavía de forma incipiente y en la medida de las posibilidades en mejorar la situación del empleo juvenil

gobernatzen duzuen erakundeetan intsumisoak zarete indarrean dauden legeekiko respecto a la enmienda de upyd creemos que debiera de debatirse

apoyaremos dicha enmienda además viniendo de usted señor maneiro que siempre defiende que todos los españoles tienen que ser iguales y que son iguales hombre plantear ese contrato específico aquí en euskadi solamente para difícilmente

insta al gobierno vasco a presentar semestralmente en el parlamento el reflejo de las medidas adoptadas en relación al empleo y mejora de la empleabilidad eta espero dugu

señora presidenta buenas tardes a todos bien desde este grupo no hemos presentado ninguna enmienda a esta moción porque

por una prioridad que yo creo que es una prioridad para todos motivada por una preocupación

las tasa de empleo juvenil en euskadi la motivación decía parece que es

el enésimo pronunciamiento en contra de la reforma laboral y no voy a volver a hablar de la reforma laboral porque creo que los debates han sido profusos en esta cámara

sobre esa reforma laboral de forma clara y no voy a volver a hablar de esa reforma laboral aunque en su moción únicamente hable de ello los tres puntos los tres tienen como objetivo la reforma laboral y eso que la interpelación que usted le presentó al señor lehendakari

el señor toña sobre las medidas era sobre las medidas que estaba adoptando el gobierno vasco para combatir la precariedad laboral de los jóvenes y la tasa de paro de los mismos y usted hoy aquí tampoco es que haya hablado mucho de ello viene a recoger lo que dice en la moción y además usted cuando presenta la moción lo que hace es recoger el guante que le lanza el señor toña el consejero la verdad que ha resultado ser un alumno aventajado del estilo del gobierno urkullu

en el que el culpable de la precariedad laboral siempre es ajeno al gobierno vasco siempre el culpable de la alta tasa del desempleo juvenil en euskadi no está en lakua nunca siempre

que en el noventa y nueve por ciento de los casos suele ser el gobierno de madrid prácticamente si uno leía la contestación a la interpelación que hizo el señor toña la culpa de la precariedad

o en su caso también llegó a decir que los empresarios pero en ningún caso hizo análisis de las medidas adoptadas

eficaces o no más allá de hacer una relación de las mismas es verdad se ha dicho aquí que tenemos una tasa

menores de veinticuatro años es decir casi es cuarenta por ciento estaban es situación de desempleo

pero desde luego son superiores a la media europea el gobierno vasco hoy aquí lo ha vuelto a decir la representante del partido nacionalista vasco en su plan de empleo para este año dos mil quince

con un presupuesto que rondaba los veintitrés millónes de euros en fomento del empleo juvenil

afectadas y lo primero que cabría preguntarse es si realmente han sido eficaces estas políticas

pues no hacemos nada y punto no es posible hacer con nuestras competencias con las que tenemos más allá de reclamar continuamente nuevas competencias con las que aquí tenemos que son muchas medidas diferentes para aumentar esas tasas de empleo juvenil

únicamente en su moción se refiere a la reforma laboral y distintos estudios entre los tres puntos se refieren a la reforma laboral

más allá de que estudie lo relacionado con la reforma laboral pues bien le voy a leer unas frases los jóvenes saben que tienen muy difícil

la crisis incrementará los problemas de emancipación de la juventud vasca que se verá obligada a aceptar condiciones de trabajo más precario pero estas frases no corresponden a este año dos mil quince

al año pasado corresponden a un estudio del observatorio vasco de la juventud del año dos mil ocho

quién lo gestionó los años anteriores quién no estaba llamado

quién era el responsable entonces de alcanzar mayores tasas de empleo juvenil qué se hizo

de españa entonces en manos socialistas que tienen la varita mágica para todo qué se hizo para aumentar esas tasas de empleo

entonces la reforma laboral satanizada no estaba en vigor

sobre todo entre los que cuentan con estudios universitarios de hecho el desempleo ante los titulados universitarios es dos veces más alto que la media de la unión europea invertimos mucho en educación y bien invertido está tenemos los jóvenes

pero no evitamos esas tasas de desempleo tan elevadas y qué hemos hecho para evitarlo según un estudio del consejo de juventud de españa que conocimos hace poco

siendo el porcentaje de jóvenes emigrados sobre el total de la población juvenil superior al de la media española

no cuentan con oportunidades no debiera el gobierno vasco plantearse a hacer

oportunidades no se debieran adoptar medidas para evitar que jóvenes preparados se vayan de euskadi y luego no vuelvan para que los que se van buscando formación vuelvan

juventud pone también de manifiesto dos cuestiones importantes en primer lugar pone cifras

va a suponer para euskadi económicamente hablando una pérdida cercana

casi cuatro coma cinco millónes de euros teniendo en cuenta lo invertido en educación y los impuestos que van a dejar de aportar a las haciendas vascas en segundo lugar

de ahora al dos mil veinticinco si se cumpliesen determinadas condiciones

que es lo que se les pide desde el gobierno vasco pasan por medidas que favorezcan aumentar la tasa de emancipación el acceso a la vivienda y aumentar las tasas de ocupación

es muy alta estamos casi diez puntos por encima de la media nacional y es verdad

en el gobierno de españa el ministerio después de un acuerdo que se tomó por parte del ministerio de empleo y seguridad social y los consejeros de empleo de las comunidades autónomas

subió la edad para acceder al sistema nacional de garantía juvenil a los veintinueve años y eso ha permitido que un total de

menores de treinta años del país vasco se hayan visto beneficiados y también dentro de la estrategia de emprendimiento y empleo joven

nosotros aquí en el pleno monográfico que hubo sobre empleo también pusimos encima de la mesa determinadas medidas y creo que esa es la senda que hay que seguir utilizar nuestras propias competencias para generar oportunidades no echarle la culpa a la reforma laboral

sino que utilizando el autogobierno del que disponemos generar las condiciones para disminuir las tasas de empleo juvenil que es verdad que son inaceptables para permitir una mayor calidad en el empleo y en los salarios y sobre todo para evitar que jóvenes

yo creo que si bien es verdad que pueden estar relacionados los dos debates que se han dado aquí por una parte el debate que hoy eh bildu traía

buscar la raíz del problema problema de la precariedad laboral de la juventud global

no solamente lo dice eh bildu que es la reforma laboral sino que el propio consejero de empleo también así lo reafirmó y nosotros entendemos

el problema de raíz hay que tomar medidas que atajen ese problema de raíz y por eso traíamos hoy aquí este debate con unas medidas concretas no de críticas señora llanos a la reforma laboral también he dicho en mi primera intervención que ya hemos hablado sobre este tema el parlamento se ha posicionado al respecto si no vamos a ver como hacemos frente o que medidas podemos buscar para

nefastas que está trayendo la aplicación de esa reforma laboral y ese creemos que es el debate y ese

que eso no exime al gobierno de que también paralelamente al mismo tiempo tiene que desarrollar políticas activas de empleo eficaces y por ahí va un poco el otro tema que se ha sacado aquí que es el plan de empleo

de la enmienda de transacción que se ha hecho entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco porque creemos que es una declaración de buenas intenciones en el primer punto se dice seguir con los agentes juveniles trabajando

de hecho ha entrado en este parlamento una solicitud de comparecencia del propio consejo de juventud para explicar

y seguiremos hablando y también el propio consejero esta misma semana

el deseo de que los programas de empleo sean de forma consensuada por lo tanto seguiremos hablando de los programas y de los planes de empleo y el segundo punto un poco viene

a reafirmar esa idea a exigirle al gobierno a que traiga

en lugar de cada año como lo hace ahora que sea semestralmente

como he dicho al principio a la raíz del problema este mismo lunes también

los datos del programa de empleo de la evaluación de empleo del año pasado la señora arregi aquí ha dado algunas cifras yo no voy a volver a repetirlas

formación para el empleo juvenil cuatrocientos ochenta empleos creados creemos que esto es suficiente pues efectivamente ante ese diagnóstico que eso sí seguro todos compartís y todas las que estáis aquí compartís conmigo creemos que

muchísimo más también la señora arregi ha comentado que el pasado pleno de política general el propio lehendakari urkullu entre los pilares que destacaba o las prioridades que destacaba era

sí un cero coma veinticuatro por ciento más para el programa lehen aukera esas son las prioridades del señor urkullu o por lo menos así lo trasladó ojalá esté

y sea mucho más el presupuesto que vaya a incorporar me gustaría volver a lanzar nuestro deseo

y de colaboración veo que es muy difícil que el resto ha cerrado la puerta y que hoy

saldremos de aquí con otra negativa a terminar con esta lacra que en definitiva no solo la sufre la juventud vasca

para toda la sociedad simplemente terminar me gustaría que

para con el gobierno navarro en este tema también y así voy a leer uno de los puntos del programa del gobierno navarro que se compromete a expresar una posición contraria a la reforma laboral vigente

jurídico para conocer en su caso las posibilidades del gobierno de navarra de compensar aunque fuera parcialmente sus impactos sobre el trabajo

el asunto que han traído hoy aquí es un tema muy importante y yo se lo agradezco porque realmente

que no acaba hoy que tendrá continuidad seguramente porque el combate contra la precariedad no va a ser fácil seguramente ustedes han planteado en términos

y realmente es un problema serio españa presente la tasa de temporalidad más alta de europa después de polonia

al fraude generalizado en la contratación yo creo que es difícil que incluso con un contrato único esta cultura instalada pueda desaparecer

y son dignas de estudio pero van a exceder del tiempo que tenemos aquí solo quiero decirle que en europa no hay ningún país que tenga el contrato único y que de todas maneras esto en su día los precursores de esta idea es una fundación que se llama fedea patrocinada por el ibex que eso

y decir también que en todo este recorrido los socialistas seguramente

que a lo mejor también han contribuido cómo no a esa precarización digamos que hay una tendencia a tratar las relaciones laborales como si fueran

una cínica ficción de que hay una simetría entre el capital y el trabajo y por lo tanto esa tendencia esa cultura sentada es lo que hay que desterrar y eso es a lo que nos aprestamos los socialistas y en un cambio de ciclo esperamos llevar adelante políticas

no van a desterrar la precariedad del todo sí por lo menos el compromiso es que en una legislatura podamos colocarnos al menos en la media europea que sería un objetivo razonable por otra parte la reforma laboral se podrá ensalzar o se podrá denostar

su aplicación se han registrado digamos indicadores realmente yo creo que preocupantes

de hecho el despido la transformación de puestos de trabajo indefinidos en puestos precarios

empleo como consecuencia de las políticas de austeridad es decir es todo una política en general no solo la reforma laboral sino también las políticas de austeridad

nos conjuramos para desterrar ese tipo de influencias y a la vista de lo que la historia hoy día nos demuestra

y buscando instrumentos que sean efectivamente capaces nosotros al gobierno si hacemos una enmienda de transacción que puede parecer tan low cost

llevado a cabo transacciones y acuerdos que conminaban y emplazaban al gobierno a llevar adelante determinados acuerdos que los he recordado aquí y que el gobierno no los hace

un grano de arena es decir por ejemplo en la contratación pública un asunto que está también en los debates de esta cámara sobre cláusulas sociales sujeciones a convenios eso no es más que fortalecimiento de los convenios colectivos y por lo tanto de la negociación se puede hacer he citado un acuerdo

a no precarizar los empleos y demás no tenemos noticia bueno ya sabemos que el gobierno en este tipo de cosas

digamos con una cierta no se si dilación pero por detrás de los tiempos que esperamos los grupos de oposición en todo caso sabemos que es una

problemas serios sobre todo porque realmente no estamos hablando solo de instrumentos jurídicos sino estamos hablando como digo de esa cultura del fraude y creemos que el gobierno por concretar debiera de fortalecer los medios necesarios en inspección de trabajo para luchar

uno de los origen es más claros de la precariedad nada más eskerrik asko itxaso jauna mistoak

señor itxaso usted ha despachado el asunto del contrato único de manera un poco triste ha terminado básicamente diciendo que

fuera bueno yo le recomiendo una artículo

titulado como sigue puede el contrato único ser de izquierdas

se lo lea porque igual usted cambia de opinión para nosotros en este caso no es importante como se le defina a esta idea

como una propuesta de izquierdas o una propuesta de derechas para nosotros lo importante es que sea una medida eficaz

una medida eficaz por lo tanto le pido que para la siguiente intervención que pueda debatirse este asunto me diga algo más

es una idea de derechas que es básicamente lo que usted ha venido a decir la señora

inmensa batería de medidas puestas en marcha por este gobierno para crear empleo y acabar con la precariedad laboral que también afecta a los jóvenes vascos bien se han puesto en marcha una serie de medidas yo le pregunto por los resultados de esas medidas qué resultados hemos obtenido

con esas medidas que ustedes han puesto en marcha lo que se ha hecho básicamente es crear empleo débil y esto en el mejor de los casos lo cierto es que continua la precariedad laboral y en ese sentido tengo que decir que la transaccional que ustedes han firmado es muy coherente con sus postulados políticos y con lo que unos y otros han venido diciendo

hace una semana exactamente la señora mendia en el debate de política general dijo algo que me llamo poderosamente la atención le dijo al lehendakari que ella no le responsabilizaba por el paro existente en euskadi que era una forma de decir al lehendakari que efectivamente el gobierno vasco no puede hacer nada para crear empleo estable y digno de calidad y por lo tanto no puede hacer absolutamente nada para luchar

va en esa línea efectivamente no se puede hacer básicamente nada lo único que se puede hacer es seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora

no hay ideas de alcance para acabar con esta lacra y lo segundo que se propone es informar semestralmente a este parlamento de estas propuestas planteadas

en fin a mí me parece esto ciertamente triste me parece triste en el caso del gobierno vasco

está transaccional con el grupo nacionalistas vascos lo cierto es que la transaccional es precaria como el empleo que ustedes crean conclusiones del debate de este soporífero debate el gobierno vasco incapaz de luchar contra el paro y la precariedad laboral el gobierno vasco no tiene ideas ni propuestas novedosas con lo cual el resultado será el mismo que hasta ahora

parece que no hay soluciones tercera conclusión del debate el grupo socialista cierra filas con el partido nacionalista vasco y carece de ideas ya lo dijo la señora mendia el lehendakari no es responsable del paro en euskadi con lo cual el resultado del debate es cero es una pérdida de tiempo el partido socialista y el partido nacionalista vasco no tienen ideas

y el paro por lo tanto lo que tenemos básicamente es un gobierno inerte y el grupo socialista en fin como el grupo de esta oposición

un simple palmero de este gobierno ciertamente triste eskerrik asko maneiro jauna

y dice que es una declaración de intenciones la enmienda transaccional a la que hemos

a nosotros nos parece importante porque una de las quejas que la juventud siempre suele trasladarnos y también los representantes de la egk que usted hacía mención al tema de las rz que ya nos lo presentaron

realizan programas o que se ponen en marcha programas que tienen que ver con la juventud sin haberles tenido en cuenta o sin haber hablado con ellos por lo tanto creemos que el compromiso y

a poner en marcha este tipo de programas hablen previamente con representantes de la juventud nos parece importante y nos parece un paso adelante y para que de ello entre todos de verdad consigamos que las medidas que se implanten pues sean eficaces y se consiga mejorar la situación de desempleo de la juventud y la situación de precariedad

dentro de ese decálogo uno de los puntos sea la reforma del estatuto de los trabajadores

y modificaciones a presentar en el congreso de los diputados supongo que la siguiente legislatura digo yo dice que

mencionando varias cuestiones dentro de ese decálogo que creo que son para discutir y debatir en el congreso de los diputados más que en el parlamento vasco pero que el gobierno vasco sí que puede hacer cosas pero no nos ha mencionado absolutamente y yo sí que le he relatado una serie de programas y acciones concretas que el gobierno vasco ha puesto en marcha dirigidas concretamente a mejorar la empleabilidad de la juventud y

y muy poco o nada respecto al tema de la juventud en concreto que creo que era el objeto de la iniciativa de la iniciativa de hoy señor maneiro hablaba que la crítica a la reforma laboral está bien pero que es insuficiente y en eso estamos de acuerdo compartimos y por eso

que el gobierno estaba siendo proactivo está tomando medidas que no son

totalmente de acuerdo pero medidas se están tomando y ahí están las hemos relatados las ha venido a explicar el consejero en comisión

señora llanos la reforma laboral desde luego ayudar no ha ayudado se nos vendió como que iba a ser la panacea para la solución del tema del paro de la situación de precariedad hombre usted tendrá que reconocer que desde luego no ha solucionado

la situación en la que se encuentra españa en absoluto

estamos de acuerdo en que lo que el gobierno tiene que hacer es utilizar la competencia y las políticas activas de empleo y creemos que en ello se está actuando que tiene que continuar que habrá que seguir tomando medidas y que tendremos

conseguir que sean más eficaces y acabar con la situación en la que nos encontramos totalmente de acuerdo pero el gobierno trabajando está y compartimos con usted cuando decía que

y conseguir medidas eficaces en este sentido y para mejorar también las condiciones laborales de la juventud cómo no en ello continuará empeñándose el gobierno y el grupo que le sustenta y para ello tendemos la mano desde ya

gracias señora presidenta y señora zulaika no hago maximalismos aquí

a la adopción de medidas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes no se va a dar un portazo a su propuesta que no es lo mismo no sé

lo que opina la sociedad vasca lo que opinan los jóvenes

maximalistas diciendo que si se da un portazo a una iniciativa suya se está dando un portazo a que apoyemos el resto de los grupos

no se da un portazo a su iniciativa y se lo he explicado además no he hecho enmienda precisamente porque usted

parecían empezar un acuerdo de gobierno el señor toña lo dice la culpa la tiene la reforma laboral pues ya está pues la reforma laboral

y no pido nada más con relación al partido socialista

hombre ocho años hasta el dos mil doce y antes del noventa y seis ni le cuento cómo que alguna responsabilidad

mucha y hablan ustedes de indicadores preocupantes no indicadores preocupantes

cuando el gobierno de mariano rajoy llega eso sí que eran indicadores preocupantes y hablan de la reforma laboral y aquí se ha expuesto que la reforma laboral

que ha servido para flexibilizar el mercado de trabajo y no voy a entrar a hablarlo pero desde luego en este momento hay menos paro

y estábamos en los puestos que estábamos en europa y ahora estamos en los que estamos si usted cree que no ha habido una evolución mira no hay peor ciego que el que no quiere ver

porque si uno los tiene así es imposible pero vamos que me diga

como en el año dos mil doce ya le digo pues un bastón porque otra cosa no le puedo decir ha relatado medidas claro es que solo faltaba que no las hiciéramos lo que hace falta es analizar si esas medidas son las adecuadas porque cuando uno se plantea crear empleo a catorce mil jóvenes y luego el resultado es el que es pues habrá que plantearse si realmente son eficaces

y plantear otras medidas diferentes porque pedir competencias está muy bien

entonces eso de pedir competencias cuando no sabemos ejercer las que tenemos pues hombre primero aprobamos tercero hacemos bien lo que ya tenemos

medidas hay cuatro ejes desde luego presupuesto también insuficiente

en el debate presupuestario pero que no están generando las expectativas que el propio gobierno vasco da eso es una realidad y eso es lo que tienen que hacer no cuando se habla de lo de fuera ahí sí se critica ahí sí se analiza

únicamente se hace una relación de lo que se hace pero no se valora ni se analiza si se está haciendo bien o si se podría hacer de otra manera

reducir las tasas de desempleo en general y las de juvenil en particular porque son más elevadas como le digo que la media europea aunque estemos mejor que en el resto de españa con relación a la enmienda de upyd mire es verdad que esto

que puso de acuerdo a un montón de partidos políticos al partido popular al partido socialista a los de izquierdas y al propio partido nacionalista vasco que aunque aquí la señora arregi no lo ha dicho ya le digo un experimento de burócratas lo llamó entonces

mejor para conseguir el objetivo pero ya le digo que tuvo un rechazo donde lo tuvo y que les animo a que si confían en eso que sigan planteándolo y con relación a las enmiendas pues mire

pues así su enmienda sí y la paz en el mundo que está muy bien

y las dos juntas ya pues son más una declaración institucional que una

con los jóvenes y que de acuerdo con ellos hagan las medidas fenomenal yo creo que en eso también podemos estar de acuerdo todos pero bueno ya le digo eso es más una declaración institucional

que una verdadera propuesta

son ustedes el sostén del gobierno vasco para no cumplir y si no cumplen

si no cumplen qué más le da que se lo digan cada seis meses cada tres meses o cada mes la cuestión es que lo que hay que pedir
no es que nos informen de que no cumple sino pedirles que cumplan nada más muchas gracias eskerrik asko

trabajar para mejorar la vida de las cuidadoras

trabajar teniendo en cuenta la diversidad sexual la identidad del género y trabajar contra la lesfobia la transfobia el racismo y la fobia contra las personas discapacitadas fomentar el empoderamiento de las mujeres así como impulsar la creación de redes y colectivos de mujeres bi